esaten zenuen bezala edo ez habrá que preguntar uno a uno porque igual no somos los cuarenta y ocho

legebiltzar honetan legebiltzar honetan en este parlamento no ya una moción que también tiene su importancia y relevancia o con una proposición no de ley no votando ley ley

todos los miembros del partido nacionalista vasco también algunos de ea que están ahí representados no son ellos pero sí el señor matute

protagonizando aquella votación tan tenían claro el derecho a decidir que tres votaron a favor y tres en contra tres a favor y tres en contra

raquel peña y joseba alvarez en contra y el séptimo se volvió a reorganizar eta

tres a favor tres en contra el resultado es cero

la ley de consulta consulta a la que usted se refiere consulta en junio del dos mil ocho cuántos votos a favor

seguro que ni recordáis a que no alguien sabe un voto un voto esa es la memoria

y venís con una encomienda un emplazamiento para que decidamos como pueblo etcétera etcétera

eta hauek dira gure hiru oinarriak porque después también hay gente que dice que el pnv se tiene que aclara que tiene que decir vuelvo a referir

doscientos cincuenta y cinco a doscientos sesenta y uno del programa decimos el parlamento vasco proponemos

tocaría compartir esta es nuestra posición compartir

a ser consultada y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada esto es difuso

no se entiende lo que es el derecho a decidir la constitución y el reconocimiento de un sujeto político no se entiende

segundo punto el método de resolución de los conflictos se asienta en el diálogo en la negociación en los más amplios acuerdos entre las fuerzas políticas o en su defecto

no se entiende que es la búsqueda desde el diálogo la negociación el consenso más amplio posible pero que tampoco cabe

y mayoritariamente defina este parlamento o el conjunto de la ciudadanía es tiene que ser la guía de comportamiento y de respeto

y el tercer punto evidentemente no es una glosa de la unilateralidad lo que dice es que el principio democrático más básico bastantes comparecientes en la ponencia de autogobierno que se han referido a este principio democrático machaconamente y no necesariamente por ponentes llamados por fuerzas nacionalistas que también ha habido gente de otra obediencia ideológica que han subrayado el principio democrático que dice

lo que conlleva a que los actores políticos e institucionales concernidos deban negociar los ajustes necesarios que den respuesta a la expresión clara de esa voluntad egibar jauna amaitzen joan

más tres menos tres igual a cero los del partido nacionalista vasco y entre otros empezando por el lehendakari urkullu y este que os habla votamos que sí

no tuvimos una espantada en nuestra bancada y unos se marcharon y votaron que no eskerrik asko

gracias señora presidenta eguerdi on guztioi señor lehendakari señores consejeros año

información del periódico reflejando debate parlamentario cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí este es uno de nuestros males

sigue el dinosaurio de los debates permanentes de la noria que se mueve pero no avanza en este parlamento o lo que es lo mismo dicho de otra manera mucho menos literaria siempre que ocurre igual sucede lo mismo

se dice lo mismo es inevitable que reproduzcamos en este parlamento no solo en los debates sino el propio contenido

y no avanzamos y seguimos paralizados siempre con la misma matraca cíclicamente con una o con otra envoltura

hoy toca a los señores de bildu otros días les ha tocado a ustedes se trae a esta cámara este debate utilizando uno u otro eufemismo

diciendo lo mismo con distinto envoltorio siempre diciendo lo mismo no avanzan ustedes no progresan

ni de ninguna otra manera y nosotros el resto los que no somos independentistas también inasequibles al desaliento

con más paciencia que ganas y asistimos a sus navajazos hoy toca el de bildu al partido nacionalista vasco se lo tengo que reconocer

intelectual porque ustedes ustedes se reparten los papeles o sencillamente se reparten los reproches

el y tú más el cuál es tu hoja de ruta la mía es esta el yo voy más rápido el tú vas más lento el tú no dices lo que tienes que decir es que vosotros votasteis no sé qué es que tú eres más alto tú eres más bajo es que tú te lo crees tú eres independista y tú no pero qué broma es esta

qué espectáculo nos hacen padecer ustedes cíclicamente en este parlamento pero no nos hemos dado cuenta de los problemas que hay ahí fuera

no nos hemos dado cuenta de la reproducción constante del día de la marmota en esta cámara

lo lejos que están este tipo de debates esta forma incluso de debatir este contenido del debate de la realidad

de verdad están tan lejos de verdad vivimos en países tan diferentes de verdad ustedes creen que la prioridad de esta tierra es este y tú más entre nacionalistas es este espectáculo de navajeros

que este debate aporta algo en positivo a euskadi es que alguien se cree realmente

incluso para aquellos que son nacionalistas incluso para muchos que se consideran y se definen como independentistas de verdad que este es el espectáculo este es el debate que esta cámara quiere proyectar a la ciudadanía

en el año dos mil quince no tenemos trabajo por hacer no tenemos debates que reproducir no tenemos acuerdos

como para que este sea su debate y que todos tengamos que le vamos a hacer que entrar en él pues miren

que le vamos a hacer para ustedes y solo tenemos una hoja de ruta

la democracia las leyes esas que si no gustan se cambian

esas que si se creen que son ineficaces o que no responden a una realidad social y política se cambian

no se rompen porque creemos que en un estado democrático social de derecho como es este

solo desde el respeto a las normas de las que nos hemos dotado para convivir podremos seguir conviviendo podremos seguir progresando podremos seguir creciendo como sociedad podremos

una respuesta útil a sus problemas pero insisto solo desde

de la legalidad y desde su modificación si es que se quiere modificar seremos capaces de

mucho más útil para los ciudadanos donde la convivencia sea

de cualquiera que se dedique a la política

se entiende lo que ustedes escriben lo que sucede es que no se entiende lo que quieren

hay que hacer un esfuerzo es verdad porque el eufemismo que ustedes utilizan

con el señor arraiz de bildu es una utilización permanente

lingüística para no terminar de mojarse y decir lo que realmente quieren eso es cierto insisto se entiende el pueblo vasco es un sujeto político

su futuro por supuesto que es un sujeto político ya se lo he dicho en muchas ocasiones no sé por qué usted cuestiona que euskadi

claro es un sujeto dotado de instituciones políticas que toman decisiones sobre el ámbito que le compete

por qué el partido nacionalista vasco se empeña permanentemente en cuestionar la capacidad política

consideración de sujeto político con plenos derechos y cuestionarlo continuamente

el método de resolución de los conflictos qué conflicto la disparidad de criterios

es conflicto permanente una sociedad plural una sociedad plural es conflicto la democracia la convivencia en democracia es conflicto

de afrontar la realidad y tomar decisiones pero ese conflicto se resuelve solo dentro de la legalidad solo dentro del acuerdo dentro de la sensatez

a los intereses generales de la comunidad autónoma vasca de los vascos en definitiva que son muy plurales porque todos los intentos de homogeneizar acaban siempre de la misma manera saben cuál

esta es la parte que más me fascina el punto tres el principio democrático más básico exige dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante lo que conlleva a que los actores políticos y las instituciones concernidas deban negociar los ajustes necesarios que den respuesta a la expresión clara de esa voluntad hombre no es que sea un galimatías

y llevamos toda la legislatura pidiéndoles que se mojen y que efectivamente digan lo que realmente quieren

ustedes quieren la independencia de euskadi sí o no

porque estos señores sabemos que sí utilizan a veces eufemismo pero quieren la independencia de euskadi bien

tiene una oportunidad magnífica salir aquí y decir mi objetivo en política

dígalo y luego ya negociamos hablamos discutimos en la ponencia o donde usted quiera pero usted qué quiere

sería importante saberlo para poder por lo menos jugar en igualdad de condiciones

queremos buscar lo que nos une sabemos lo que nos separa pero queremos profundizar en lo que nos une queremos buscar la colaboración el entendimiento

no queremos ser más pequeños y más débiles creemos que eso es bueno para euskadi un futuro de entendimiento no con el resto de españa que también

primero entre vascos porque la diversidad estando en el conjunto de españa y siendo algo positivo también está en euskadi

absolutamente diversa plural heterogénea y nosotros creemos que es una de sus grandezas y que alguien pretenda imponer homogeneizar una euskadi sobre otra es un profundo error que solo nos lleva al enfrentamiento y a la tensión y por responder

a la pregunta del señor arraiz usted preguntaba qué es lo que quieren

o qué van a hacer ustedes yo se lo digo desde los gobiernos de álava y vitoria desde luego no a la independencia de euskadi y allí donde tengamos la oportunidad también de defender

lo haremos y los votos del partido popular estarán encaminados a eso porque nosotros creemos que es mucho mejor

antes que el enfrentamiento lo creemos creemos que es mucho mejor buscar lo que nos une a los vascos que permanentemente reproducir debates que solo abundan y ahondan en lo que nos separa qué le vamos a hacer lo creemos porque nosotros creemos que es mucho mejor trabajar por ser más competitivos

más libres y tengan más oportunidades que buscar una euskadi más pequeñita con un ombligo más grande

aprendamos de la experiencia aprendamos todos de la experiencia en este mismo parlamento y el señor egibar se lo recordaba de otra manera y con otra intencionalidad

y sabemos dónde nos han llevado determinados posicionamientos sabemos dónde nos ha llevado la

nos ha llevado más crispación a más enfrentamiento la sociedad vasca está harta yo creo honradamente que está harta que está cansada del enfrentamiento de sus políticos y está

gracias presidenta yo creo que se equivoca usted señor sémper no le ha preguntado a usted nada al señor arraiz le importa un pimiento se lo preguntaba al partido nacionalista vasco que era el objeto

de si estábamos invitados de verdad o no a subir a esta tribuna a participar en un debate

porque a mí desde pequeño me enseñaron que en peleas entre familias mejor no meterse pero en fin yo creo

lo que nos parece y usted nos trae aquí para hacer un debate que sinceramente usted sabe hemos tenido decenas de veces en esta cámara

decenas de veces y lo único nuevo probablemente sea su presencia aquí

viejo de siempre sobre este tema y todo esto por qué

en un momento electoral muy concreto una pelea entre nacionalistas

más radical en sus aspiraciones nacionalistas para ver quién la tiene más grande la voluntad soberanista digo y se atreve a decir la palabra independencia o a poner fecha a la dichosa consulta en la interpelación de la que procede esta moción bildu actuando de esquerra republicana pero sin barretina propuso al lehendakari es decir al pnv

por el presidente de la generalitat una dinámica que sabemos ha fracturado a la sociedad catalana por cierto cada vez más y ha tirado una legislatura a la basura en plena crisis para qué para llegar a ningún sitio

esto es ir hacia el despeñadero exactamente al borde que se encuentra ahora mismo cataluña el señor arraiz incluso se sacó el conejo de la chistera de rescatar el plan ibarretxe por cierto se les veía a ustedes encantados en la ponencia de autogobierno escuchando al señor ibarretxe y lo saca como punto de partida a ver si cogía los jeltzales en el renuncio

porque el plan ibarretxe para el pnv es tanto un hito a conservar y defender de palabra como una experiencia de la que salieron absolutamente escaldados

pero que ellos tenían su propia hoja de ruta que no quieren verse en el brete de quedarse colgados de la brocha como se ha quedado el señor mas y mucho menos rehenes de ustedes

en cataluña y luego usted ha dicho cosas curiosas quiere saber si los ayuntamientos van a tener mayorías para impulsar el derecho a decidir pues a buenas horas ahora me entero yo que las elecciones municipales de mayo

para hablar del urbanismo de la vivienda de la atención a los ancianos de las residencias de la sostenibilidad no no son para decidir

fíjese usted acaban de descubrir ustedes una nueva modalidad de elecciones municipales que creo que no es en lo que los ciudadanos vascos están pensando precisamente ni mucho menos

y ahora le piden al gobierno una consulta antes de que termine la legislatura

pero cuyo contenido evitan precisar a ver si cuela pero que por enunciado y por la procedencia pues es evidente de lo que habla del derecho a decidir y de la independencia si yo no les niego a ustedes la claridad y tampoco nos la negaran a nosotros por eso le decía que estamos un poco aquí de invitados de piedra esto lo podían haber solucionado ustedes en la sabin etxea o en su sede

porque aquí las palabras lo aguantan casi todo los hechos ya no tanto porque es muy sintomático que en su moción

la consulta y ya después el contenido el acuerdo entre diferentes el acuerdo entre las fuerzas políticas entre distintos sectores de la sociedad vasca esta sociedad que yo entiendo que les disguste pero es que es cabezonamente diversa plural y distinta y lo va a seguir siendo porque sabe usted perfectamente que lo que usted propone más allá del efecto electoral que a su electorado le podrá servir

cuando lo que pretenden realmente es negar esa sociedad plural y diversa que sigue existiendo y que lo va a ser así yo entiendo que a ustedes les gustaría otra euskadi una en la que todos fuéramos como ustedes

para compensar un poco pero a nosotros no es eso lo que nos gusta es decir no vamos a entrar en una subasta de ocurrencias ni a un concurso de proyectos ni creemos en ese derecho a decidir en abstracto que no existe en ningún país democrático

y que solo se utiliza para camuflar lo que de verdad se quiere decir la independencia la secesión que tampoco es un derecho de un país democrático pero bien empecemos por la claridad

dice en su moción que la finalidad de la consulta es hacer a la ciudadanía vasca de álava bizkaia y gipuzkoa dueña de su propio futuro

existe gracias a un estatuto de gernika y a una constitución que ustedes combatieron

gracias a eso esa sociedad hace mucho tiempo que decide su futuro y lo que debieran hacer es escucharla de vez en cuando escuchar lo que dice y esto

y dejen de competir a ver quién es más radical y consecuente en su nacionalismo y dejen de marear a la sociedad vasca con sus aspiraciones y metas porque todos tenemos las nuestras pero no es así como se construye una sociedad dejen de marcarse tantos y de dibujar vías hojas de ruta en el aire y atiendan un poquito más

muchas veces en esta cámara pero se lo vamos a repetir otra vez los socialistas creemos en el autogobierno profundamente como la mejor fórmula de progreso y la convivencia en euskadi

dinámico adaptado a los cambios de la sociedad vasca y al mundo que nos rodea y por eso antes de que quieran seguir mareándonos con iniciativas que valen para estas peleas y para poco más pues yo se lo voy a repetir

no es un fin en sí mismo es un instrumento y nosotros pensamos que el más adecuado para llevar a cabo los ideales de justicia de igualdad y de desarrollo sostenible y creo que nadie puede negar los avances de todo tipo que en estos treinta y cinco años ha tenido esta sociedad ni siquiera ustedes los pueden negar y estamos dispuestos a abordar

a la vista de la experiencia y de hecho ya hemos presentado una propuesta de reforma de la constitución en sentido federal que entre otros aspectos ayudará a encauzar

pero para que quede claro por si no lo estuviera suficientemente nuestro objetivo es profundizar en el autogobierno por supuesto pero para convivir mejor dentro de españa

ese no es nuestro modelo ni lo va a ser nunca porque pensamos que el autogobierno tiene que servir para que la gente viva mejor y para que viva mejor dentro de españa y dentro de europa claro verdad

y por cierto para ese viaje que quieren hacer no cuenten con nosotros ni unos ni otros si piensan que el autogobierno es una especie de paso previo a la independencia

y que tanto les pone a nosotros nos ponen otras cosas nos pone la igualdad

no levantar fronteras no cavar trincheras ni nacionales ni identitarias ni de ningún tipo y para lo primero tendrán nuestro apoyo pero desde luego para ir en otro sentido con otras iniciativas como esta

baieztatzea no se va a cumplir el programa electoral

nuestra pregunta es clara y concisa la va a haber en dos mil dieciséis eh bilduren partetik borondate osoa egongo da

para poder decidir aquí en euskal herria sobre todo lo que afecta a todas las vascas y a todos los vascos eta orain

de veto y no hay veto que valga señor egibar no estamos hablando de ningún veto estamos hablando del cumplimiento

y de la utilización de los procedimientos legales perfectamente establecidos para modificar las leyes que cada grupo político en función de sus mayorías o minorías pretenda llevar a cabo no es ningún veto es democracia es la legalidad vigente y evidentemente en este caso es la constitución española efectivamente toca repetir lo que llevamos repitiendo

sémper de noria de dinosaurio de los de debates que permanentemente se repiten

a repetir lo obvio no estamos hablando de ningún veto sino que estamos hablando del cumplimiento estricto de la legalidad vigente que todos sin excepción debemos cumplir

y ustedes hablan de quiero yo quiero a mí me gustaría nuestra propuesta es esta ya

de una cosa que igual todavía no se han dado cuenta de ella es que ustedes están en minoría

minoría están en minoría para modificar la constitución española

con sus propuestas permanentes modificar la constitución española modificar el modelo de estado etcétera etcétera y para llevar a cabo esas reformas ustedes están en minoría y tienen que asumir esa minoría no es ningún veto es cuestión de mayorías y de minorías ustedes

muy bien tratados y han logrados grandes ventajas de todo tipo pero en todo caso para llevar a cabo estas reformas

para tratar de modificar la ley de territorios históricos a continuación debatimos la reforma o no de la ley de territorios históricos es posible que la iniciativa de upyd no salga adelante

a una mayoría de parlamentarios para impulsar esa reforma nosotros proponemos la supresión de las juntas generales de los territorios históricos o de las diputaciones estamos

a una mayoría de parlamentarios para llevar a cabo esas reformas no es ningún veto es que estamos en minoría y queremos llevar a cabo muchas reformas nosotros mismos queremos reformar la propia constitución española para ir hacia un estado federal simétrico y solidario

en el congreso de los diputados para poder conseguir esos objetivos pero no es ningún veto son las reglas de la democracia y por lo tanto ustedes tienen que que están en minoría y sí hay que repetirlo permanentemente aunque nos parezca que es una noria aunque parezca que repetimos siempre los mismos argumentos cumplimiento estricto de la legalidad vigente una hora y media por lo tanto dedicada al rifirrafe nacionalista venía a decir el señor sémper bueno igual tampoco es tanto tiempo hora y media la podemos dedicar igual no tenemos demasiado tiempo pero hora y media se puede dedicar

dedicamos hora y media en volver a debatir sobre los asuntos que interesan al nacionalismo sobre sus riñas sobre sus riñas familiares sobre sus guerras fraticidas no hay ningún problema seguramente no hay ningún problema quizá seamás grave

no termina de concretar qué es exactamente lo que quiere que por cierto

el partido nacionalista vasco no concreta su propuesta yo creo que lo que el partido nacionalista vasco quiere es seguir viviendo del cuento

pero yo creo que lo que sobre todo pretende más que concretar una fechar para alcanzar la independencia lo que sobre todo quiere

es seguir viviendo del cuento nacionalista porque efectivamente les ha ido muy bien durante largos años y por eso no terminan de dar el paso de decir queremos la independencia

en todo caso como decía aun siendo grave que el partido nacionalista vasco no concrete su propuesta yo creo que lo más grave de todo es que tenemos un gobierno vasco que no resuelve los problemas reales de la ciudadanía efectivamente podemos dedicar hora y media en hablar de estas cuestiones no hay ningún problema de hecho a mí me gusta no tengo ningún problema

de poder hacerlo pero lo más grave de todo es que tenemos un gobierno que no resuelve los problemas reales de la ciudadanía
el desempleo la precariedad la pobreza la desigualdad esto es realmente lo grave y de esto deberíamos estar hablando eskerrik asko maneiro jauna

eta esaten zion vienes con un folio en blanco no hay contenidos detrás de las propuestas del partido nacionalista vasco traerás frustraciones no hay contenido folio en blanco hoy se demuestra que

porque después se desarrolló todo un proyecto ya depositado en esta cámara y quien sí viene con folio en blanco es bildu

desde el punto de vista revolucionario lo que era el todo o nada

gracias señora presidenta confío en no perder la esperanza señor egibar o la ingenuidad

decir si quiere la independencia de euskadi o no confío

más nos tendríamos que enfadar nosotros de tener que estar soportando continuamente sus eufemismos

que usted ha empleado para no responder a lo verdaderamente importante ha empleado toda su intervención nos ha hablado y ha recordado cual abuelo cebolleta si otegi e ibarretxe cómo discutían los papeles

el contenido del plan ibarretxe y hasta nos ha dado un decálogo de como amar un país pero de fuste de contenido nada rompa el retrovisor señor egibar rompan el retrovisor señores del partido nacionalista vasco

no nos den lecciones de como amar al país pero qué es esto que viejuno es esto

miremos al futuro que estamos en un momento extraordinariamente complicado en el mundo un mundo que se abre que se ensancha donde todos los países de nuestro alrededor están buscando cómo ser más competitivos como ser mejores como buscar y entendimiento entre sociedades entre países entre comunidades aquí resulta que el debate es el decálogo de cómo amar al país oye y en esto toda la intervención

y resulta que estamos embarcados en una ponencia parlamentaria donde supuestamente tenemos

segunda fase puesta en común de diagnóstico ya veremos qué terminología se le da para que parezca más rimbombante

la fase propositiva y claro cuando con buena voluntad apoyamos y aprobamos la constitución de esa ponencia

asistimos a los trabajos de esa ponencia a uno a veces se le queda un poco la cara de tonto viendo

y cuál es el documento de esa ponencia que van a proponer unos y otros el plan ibarretxe

bienvenidos sean les dice en esto estamos

es un retrovisor que además no les impide verse nada más que a ellos cuando esta sociedad es mucho más plural señor egibar mire el otro día usted no asistió pero en san sebastián acudió el ministro de guindos a un foro invitado

por un medio de comunicación vasco un foro económico empresarial allí acudieron cerca de trescientos empresarios fundamentalmente guipuzcoanos pero del conjunto de euskadi

empresarios que convendremos que algo hacen por este país crean empleo y estas cosas

y luego hubo un turno de intervenciones y de preguntas saben cuántas preguntas hubo sobrecogedor sabe cuántas hubo sobre el derecho a decidir cero

sabes cuáles fueron las preguntas que el tejido empresarial de este país

sabe cuáles fueron las preguntas y los debates que se producían

a una parte al menos de la ciudadanía vasca competitividad

leyes cómo ser más competitivos en el mundo cómo funcionar mejor en un mundo más complejo y mientras ustedes ustedes y ustedes

desgraciadamente no es lo de los vascos muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

bien el señor arraiz sacaba a relucir el plan ibarretxe

lo recogía recogía el guante con satisfacción bienvenido sean

ni lo vamos a apoyar ahora tampoco si es que esa va a ser la conclusión a la que quieren llevar

me gustaría mucho preguntarle al lehendakari si el lehendakari va a asumir como propio también el plan ibarretxe

si el proyecto del lehendakari que lidera este país es aquel viejo proyecto del plan ibarretxe o es otra cosa distinta porque a la luz de las palabras del señor egibar parece que sigue estando vivito y coleando y eso a nosotros sinceramente

porque no es esa la razón por la que estamos participando en la ponencia de autogobierno nosotros no vamos a acabar en esa ponencia apoyando el derecho a decidir parece que eso está claro para todo el mundo lo vuelvo a repetir para que nadie se llame a engaño y luego el señor arraiz hablaba de una cosa que él llamaba soberanía plena ya pero es que señor arraiz eso no existe eso no existe es decir

como españa no la tiene respecto de europa como europa no la tiene en el mundo global

totales eso es un absoluto eufemismo y en todo caso la soberanía la que le toque a cada uno porque aquí son todas soberanías compartidas son solo para mejorar la vida de la gente no para dar satisfacción a ensoñaciones particulares porque

eso que ustedes y ustedes sacralizan como denominado pueblo vasco puede acabar saltando por los aires y convertirse en una comunidad dividida y fraccionada

de cataluña ese callejón sin salida que ahora ni esquerra ni mas saben por dónde tienen que trepar para salir de él porque además cuando usted le pregunta a la gente de este país sin interferencias

de los empresarios a los que hacía referencia el señor sémper hablo de lo que dice el sociómetro del gobierno vasco del mes pasado del mes de marzo lo que dicen las personas

porque lo dicen por este orden y con magnitudes muy decrecientes uno los problemas ligados al mercado de trabajo dos los problemas económicos tres la sanidad osakidetza la seguridad social la salud cuatro

cinco la vivienda y los desahucios seis la educación siete el funcionamiento y cobertura de los servicios públicos y las ayudas ocho las pensiones nueve la corrupción y el fraude en todos los caso problemas en los que el gobierno vasco y esas instituciones que usted dice que se tiene que dedicar el derecho a decidir tienen responsabilidades muy concretas

y saben ustedes dónde aparece eso que a ustedes les parece lo más importante que puede pasar pues en el puesto número diez como preocupación del tres por ciento de los ciudadanos encuestados ese es el verdadero nivel de preocupación de inquietudes

como propios que tiene este país y el suyo es el de enseñar el de partido

pero no es el problema que la gente siente como suyo yo entiendo que ustedes lo usen

y plaza por plaza pero ya me preocupa más que un partido de gobierno como el pnv

seguirles la ola por eso insisto en preguntarle al lehendakari urkullu si el plan ibarretxe es su plan o lo va a ser

gracias presidenta con esta moción que paso a defender

parlamento inste al gobierno vasco a presentar a la cámara antes del treinta de septiembre de este mismo año un proyecto de reforma de la ley de territorios históricos que tenga

eliminar las duplicidades los solapamientos y las ineficiencias hoy día existentes en el entramado institucional vasco poder disponer de unas instituciones más eficientes

de los recursos públicos racionalizar clarificar y optimizar el reparto competencial entre el gobierno vasco y las diputaciones forales y todo ello para en última instancia

al conjunto de la sociedad vasca con el segundo punto lo que proponemos es que este parlamento inste al gobierno vasco a impulsar y defender todas las iniciativas

unificar la fiscalidad vasca y configurar un único sistema fiscal en euskadi vaya por delante que

surge de una interpelación que lo que básicamente planteaba al gobierno vasco era una pregunta muy concreta la pregunta era qué piensa hacer

para actualizar y modernizar el entramado institucional vasco y lo cierto es que la respuesta del gobierno fue

ni una sola propuesta para tratar de reformar el entramado institucional vasco más allá de hacer referencia a los trabajos de la ponencia sobre duplicidades

y que están realizando los grupos parlamentarios qué era lo que pensaba hacer el gobierno vasco en relación a esta cuestión cero no piensa tomar ninguna medida para racionalizar

ni proponer la reforma de la ley de territorios históricos pero tampoco ninguna otra para modernizarnos internamente y nosotros sí pensamos que hay que tomar

entre ellas la reforma de la lth medida que planteamos hoy a través de esta moción nosotros seguimos pensando que no es razonable es más que es absurdo que una comunidad autónoma como euskadi

cuatro parlamentos cuatro gobiernos tres haciendas tres políticas fiscales y doscientos cincuenta y uno municipios además de todos los organismos dependientes de las distintas administraciones y diversos órganos que existen porque existe este entramado disparatado

o la recién creada comisión de lucha contra el fraude omitiré cuál es la propuesta completa o la propuesta global de upyd para modernizar el viejuno

y me centraré en la propuesta que hoy traemos a debate en nuestra opinión la reforma de la lth bien encaminada ayudaría a poner orden en ese entramado disparatado no sería suficiente para alcanzar

ni este gobierno pero sí pensamos que la reforma de la lth ayudaría unos cuantos problemas la euskadi del siglo veintiuno no puede vivir anclada en la historia pasada y obviamente no pueden existir leyes sagradas a la reforma de la lth deberían unirse otras medidas y reformas pero esta sin ser la panacea que pudiera resolver todos nuestros males sí que pensamos que es

medida la reforma de la ley de territorios históricos lo planteamos en la pasada legislatura sin éxito por una razón o por otra el resto de grupos parlamentarios o bien votó en contra de la iniciativa concreta de upyd o bien

sobre duplicidades que analizara ese entramado y las posibles duplicidades e ineficiencias existentes pero lo cierto es que no hemos tenido éxito y nos hemos encontrado solos

y también en esta hemos presentado preguntas interpelaciones ponencias en fin veremos a ver caso pues hay o no una mayoría parlamentaria que pide al gobierno que traiga ese proyecto de reforma según informe del gobierno vasco anterior el complejo entramado institucional vasco genera incomodidades burocráticas y desigualdad entre los ciudadanos provoca solapamiento de competencias y conlleva duplicidades en la gestión de numerosas políticas públicas según ese estudio tales ineficiencias y duplicidades nos supondrían al menos cuatrocientos tres millónes de euros anuales aquel informe pero sobre todo en mi opinión la experiencia acumulada de todos estos años

y que es urgente reformarlo profundamente no solo para reducir los inmensos gastos administrativos que provoca si no también y sobre todo para modificar y clarificar el reparto de competencias y proceder a eliminar

aquellas instituciones que se demuestren innecesarias es nuestra obligación como responsables públicos tratar de impulsar todas las reformas que sean necesarias para alcanzar

que sirva mejor a los ciudadanos que mejor facilite la prestación de más y mejores servicios públicos la más viable la más razonable la más sostenible

aquella que evite o al menos no fomente gratuitamente conflictos competenciales entre administraciones se trata por tanto de racionalizar y modernizar

institucional de racionalizar modificar y clarificar el reparto competencial entre diputaciones y gobierno

tanto en la prestación de servicios como en el pago de impuestos proposamen hau osatzeko bigarren puntuan jasota dagoena proposatzen dugu

como digo para completar esta propuesta proponemos con el segundo punto pedir al gobierno que impulse todas las iniciativas y todas las reformas legales que sean necesarias para unificar la fiscalidad en euskadi para conseguir un único sistema fiscal en euskadi para conseguir que los ciudadanos paguemos básicamente los mismos impuestos

donde residamos para que las competencias fiscales dejen de residir en las juntas generales de los territorios históricos para que este parlamento no solamente tenga voz si no también voto en lo que se refiere a fiscalidad que se aplica al conjunto de la sociedad vasca

avalan esta propuesta hay cada vez más agentes políticos y sociales que apoyan esta propuesta hay cada vez más voces que dicen que efectivamente hay que proceder a llevar a cabo

reformas la euskadi del siglo veintiuno no puede depender fundamentalmente de nuestra historia pasada no existen leyes sagradas no hay cosa peor que saber que una cosa puede mejorarse y mantenerse sin embargo

necesitamos pasar de las ponencias a los hechos necesitamos pasar de la retórica a las actuaciones concretas necesitamos pasar de las palabras

que no pueden ni deben posponerse de ahí nuestra moción no hemos alcanzado ningún tipo de transacción con ningún grupo por lo tanto lo que toca es defender y es lo que he hecho esta propuesta de upyd y pedir el voto del resto de grupos para su apoyo gracias

presidenta buenos días lehendakari señorías la enmienda del grupo socialista a la propuesta que realizaba upyd viene a decir

de forma que la aprobación de la misma se produzca antes del treinta y uno de diciembre de este año y lo hacemos así porque

un sistema institucional ágil que no sea una rémora para el desarrollo de la sociedad un sistema institucional eficiente que no consuma desproporcionadamente recursos necesarios para el bienestar y el desarrollo de la sociedad vasca que evite duplicidades y solapamientos y que siendo más eficaz preste más

y los socialistas vamos a hacer lo posible para que esa reforma llegue a buen puerto con bases mínimas para el acuerdo entre diferentes y con la voluntad nítida de hacer un país más justo

más eficiente y competitivo y además un país que garantice los servicios públicos y la calidad de vida ese es el compromiso público

y ese es uno de los ejes de actuación que nos hemos marcado para poner este país en el siglo veintiuno no tengo duda de que este debate se va a producir en esta cámara

ya nos gustaría señor maneiro pero escuchando la respuesta que el consejero erkoreka le dio hace dos semanas a su interpelación yo no aprecié mucha disposición

y que fía la presentación de un proyecto de reforma a leo literalmente antes de finalizar la presente legislatura y además

el compromiso firmado con los socialistas en septiembre de dos mil trece compromiso también firmado por el gobierno vasco y por el lehendakari han olvidado ese compromiso y ni tan siquiera el gobierno ha incluido este proyecto de reforma en el calendario legislativo que nos presentó hace dos meses el calendario actualizado pues en fin que

la actitud de los nacionalistas estamos trabajando en una propuesta articulada de reforma de la ley de territorios históricos y la estamos contrastando en diferentes sectores para dar mayor solidez y coherencia a este proyecto continuado con la labor que ya iniciamos hace unos años

lo tengo que recordar yo pero fuimos nosotros los que pusimos este tema sobre el tapete parlamentario la pasada legislatura con el informe sobre duplicidades y porque además recogimos ese compromiso expresamente en nuestro programa electoral de las elecciones autonómicas y porque además incluimos expresamente

con el partido nacionalista vasco y que rubricó el propio lehendakari en septiembre de dos mil trece por tanto no hemos partido de cero en la pasada legislatura se realizó un trabajo serio y riguroso como ya decía antes el señor maneiro

nueve áreas donde se producen duplicidades y solapamientos organizativos además también duplicidades y solapamientos presupuestarios consecuencia del mal funcionamiento de nuestra estructura institucional y en ese informe

en cuatrocientos tres millónes de euros anuales en la comisión de estudio creada entonces

de todos los partidos políticos coincidieron excepto

en la necesidad de culminar nuestro autogobierno hacia dentro sobre la base de la ley municipal y de la reforma de la ley de territorios históricos por eso

los socialistas vascos planteamos en una proposición no de ley culminar aquellos trabajos establecer unas conclusiones y abordar cuantas reformas legales fueran necesarias

pero como ni upyd ni los dieciséis parlamentarios y parlamentarias socialistas sumábamos entonces la mayoría necesaria

de crear una ponencia para analizar el entramado institucional y proceder a su adecuación en todo este tiempo nos hemos encontrado con un informe del gobierno de que es más bien un contrainforme porque está ideológicamente dirigido a negar que existan duplicidades organizativas y de gasto y además

de nuestras instituciones han pasado quince comparecientes más

con unas conclusiones que los socialistas entendemos parciales y negacionistas con las que discrepamos radicalmente y así lo vamos a hacer constar por eso los socialistas vascos podemos afirmar que después del verano en esta cámara presentaremos una proposición de ley que haga posible el debate sobre la reforma de la ley de territorios históricos

una de las prioridades de su trabajo y no le voy a reprochar que presentara la interpelación al día siguiente del anuncio de la secretaria general de los socialistas vascos idoia mendia

a la vista de que el gobierno no cumplía con su compromiso de hacerlo pero sí le digo que nuestra enmienda en coherencia con lo dicho y con lo hecho hasta la fecha una declaración del parlamento sobre la necesidad de acometer con urgencia esa reforma de la ley de forma que no planteamos

aunque ambos hayan faltado a su palabra y sí quiero también dejar claro que los socialistas no vamos a cuestionar

ni las competencias de gestión de los territorios cuestión esta con la que no coincidimos con upyd como tampoco hemos podido llegar a un acuerdo con bildu ante una posición en la que ha primado el radicalismo en el planteamiento y los intereses

sobre el interés general en conseguir una mayoría para iniciar el debate nosotros mantenemos nuestra posición que consideramos además que es una posición coherente y esta reforma que proponemos no es una fijación gratuita de los socialistas sino que entendemos que es una necesidad constatable está demostrado que la estructura institucional interna que el partido nacionalista vasco puso en marcha casi en solitario además de

habitantes es una propuesta cara y produce desigualdades territoriales la cuestión que está en juego con el debate de hoy de la reforma de la ley de territorios históricos es la igualdad plena y efectiva de los vascos y vascas por encima de los territorios

y la sostenibilidad en definitiva de nuestro autogobierno esta revisión de la ley de territorios históricos a la que se oponen tan tenazmente quienes no tienen inconveniente

en canal consensos tan básicos como los de la constitución y el estatuto tendría sobre la vida de los ciudadanos y sobre los servicios que reciben efectos mucho más notorios y positivos que los que derivarían del salto en el vacío que se nos ha propuesto en el punto que hemos visto con anterioridad en este pleno los socialistas queremos revisar a fondo

somos tres territorios y un solo país y debemos de funcionar como un solo país con normas y servicios públicos iguales para toda la ciudadanía vasca

en esa reforma debería quedar clara la igualdad de derechos de toda la ciudadanía vasca por encima de la territorialidad

hacia arriba y hacia abajo porque no puede ser que una pescatera de ondarroa que tiene un puesto en donosti por ser vizcaína tenga que pagar trescientos euros al mes en el peaje

pues tendría que abonar tan solo veinticinco euros porque no puede ser que haya tres sociedades públicas gestoras de autopistas con sus políticas tarifarias

en base a la territorialidad porque además tenemos doscientos cincuenta agentes relacionados con el emprendimiento y el empleo en euskadi además de lanbide tenemos entes públicos semipúblicos

para desarrollar políticas de medio ambiente hay diecisiete entes y sociedades públicas dedicadas a la compra de suelo y a la promoción de vivienda y así

los socialistas vascos estamos empeñados en la reforma de la ley de territorios históricos porque euskadi es una comunidad con un entramado institucional complejo con una asignación de competencias no siempre bien definidas y con un reparto de recursos que no se ajustan a las competencias que tienen asignadas las administraciones

servicios y es necesario que cuenten con los recursos justos en base a las competencias que tengan un sistema como decía que es complejo un sistema envejecido que ha provocado a lo largo de los más de treinta y cinco años de estatuto de autonomía

solapamientos y duplicidades cuatrocientos tres millónes de euros anuales los socialistas vascos queremos una reforma de la ley de territorios históricos para articular una organización institucional que permita a euskadi afrontar los retos presentes y los retos de futuro de la forma más idónea

a las peculiares características de este país por eso la propuesta que hacemos los socialistas para mejorar nuestro autogobierno hacia adentro es una propuesta de igualdad y de modernidad es una propuesta para hacer sostenible un país euskadi que sin esas reformas de no serlo y hoy sea cual sea el resultado

se habrá producido sin duda un punto de inflexión respecto al debate de la reforma de la ley de territorios históricos muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

gure herriak dituen beharrizanei erantzuna emateko tresna edo bidea es decir la modificación de la lth deja de ser un medio para convertirse en sí misma

para que comprendan de una vez por todas que el pnv no sacraliza la lth

bien clarito que revisar la lth no es anatema para el pnv

para hacer que nuestro sistema institucional siga siendo válido para dar respuesta a las necesidades de la sociedad del siglo veintiuno y hacerlo además de una manera eficaz y racional y eso quiere decir que si el parlamento concluye que es necesario realizar

respecto de políticas en las cuales observa que la distribución competencial y el modelo de interacción previsto ha quedado superado habrá que hacer las modificaciones legales que haya que hacer

el borrador de la propuesta que se ha elaborado de la propuesta de la comisión vamos a recordar una vez más que la lth es una norma expresamente abierta a reformas

excluye explícitamente los planteamientos inflexibles o rígidos que pudieran resultar inadecuados por la propia evolución social económica y política del país

una eventual redistribución de competencias que se hiciera aconsejable para un mejor servicio a los ciudadanos y de hecho como se ha recordado en numerosas ocasiones

se ha modificado en muchas ocasiones eso sí la comisión arbitral dictaminó en su decisión

que en aras a la seguridad jurídica su modificación no debería llevarse a cabo mediante derogaciones implícitas sino a través de normas con rango de ley directas y expresas y fundadas y

y también nos decía el señor pastor que las cosas hay que hacerlas con racionalidad con sosiego con tranquilidad porque las leyes decía él que

yo cuando vi la iniciativa del señor maneiro y alguna de las enmiendas

llegué a pensar que algún capítulo me había debido de perder yo entre pañales y biberones

para llegar a una serie de conclusiones e intentar tejer entre todos el acuerdo lo más amplio y plural y contrastado con

en qué situación estamos en estos momentos digo que no me he perdido nada porque el señor

la ardua tarea de elaborar el borrador del informe de la ponencia

y ha sido la propia ponencia quien ha solicitado la ampliación de plazo para que los grupos podamos presentar nuestras aportaciones o conclusiones a ese borrador creo recordar que en relación con este debate en más de una ocasión hemos escuchado a algún portavoz decir que

y nos entran las prisas y queremos entrar a vivir y yo pediría o nosotros pediríamos sosiego y la misma tranquilidad a las que aludía el señor pastor porque todavía no conocemos cuáles son las conclusiones de la ponencia y tampoco se nos puede escapar que aún nos falta una ley que es clave para cerrar nuestra arquitectura institucional y me estoy refiriendo efectivamente a la ley municipal

la compartían hace un par de años desde el grupo socialista también la compartía el propio maneiro y creo recordar que también la compartía el partido popular sin saber cuál será la ley municipal que aprobemos en este parlamento pues se me antoja muy difícil que el gobierno vasco pueda adivinar

la lth porque la actualización de la lth deberá acometerse para integrar la modificación competencial que establezca la ley municipal hoy en trámite no es más racional y no más eficiente ir encajando

a través de una secuencia lógica en el tiempo y por eso nosotros habíamos presentado la enmienda que ustedes conocen

que tenemos firmado entre los dos partidos y el acuerdo

pero a reglón seguido a reglón seguido también se dice que para la total coherencia del sistema institucional

ante la ponencia parlamentaria ya constituida ponencia que velará o tomará la iniciativa para que la tramitación de dicho proyecto cuente con la agilidad suficiente o sea

las conclusiones de la ponencia y que será la ponencia quien tome la iniciativa y creo recordar que ha sido la propia ponencia quien ha solicitado la ampliación del plazo

mila esker presidente andrea señor consejero señorías

una política de austeridad una política de simplificación

una política de transparencia quién a estas alturas puede discrepar sobre la necesidad de seguir profundizando en políticas de buen gobierno

probablemente ahí nos encontremos todos una administración una competencia ha sido y es

ha sido y es la posición política que nosotros defendemos

nuestra comunidad autónoma tiene muchas peculiaridades eso no significa que sea bueno

hay algunas que son buenas y otras que son malas pero tiene muchas peculiaridades pero tiene una

institucional o político tiene una que no existe en ningún otro lugar del mundo

tienen las estructuras federales son las haciendas forales y las tenemos en españa y es el modelo institucional español

con nuestra historia tiene un recorrido un relato histórico que llega hasta nuestros días pero que a la vez siendo una de las marcas o siendo una de nuestras características históricas nosotros creemos que nuestro entramado institucional

algunos cuestionan responde realmente a un entramado

descentralizado políticamente y administrativamente donde la responsabilidad política

es compartida que este entramado institucional ha generado algún problema sí que este entramado institucional ha generado en estos casi cuarenta años de desarrollo me refiero

generado alguna ineficiencia también es cierto a ineficiencias que necesitan ser corregidas claro como sucede

mejoremos aquello que no funciona el problema no es la herramienta sino la necesidad de modernizar

de esa herramienta nosotros creemos en la europa de la integración política

administrativa y políticamente creemos en la colaboración

de las diferentes comunidades autónomas en la gobernabilidad de españa y para eso también haría falta otro tipo de reformas y

que una españa descentralizada política y administrativamente no es equivalente al despilfarro como algunos defienden no es equivalente necesariamente al mal gobierno que es propio de políticas que están mal enfocadas es decir

el hecho de que haya malos gobiernos o que se utilice mal la herramienta no quiere decir que el diseño institucional no sirva y es verdad se ha recordado aquí que hay una comisión hay una ponencia sobre duplicidades e ineficiencia que todavía no ha terminado sus trabajos

pedimos es que determine su trabajo que elabore unas conclusiones y que sobre las mismas podamos debatir y tomar decisiones no poner el carro

integradora como entes integradores de su diversidad desde su pluralidad porque igual que creemos en el respeto a la diversidad de españa

a la diversidad de euskadi a la diversidad en euskadi defendemos por lo tanto la convivencia entre modelos diferentes

las diputaciones forales y lógicamente las haciendas forales como han cabido en nuestra historia insisto

modernización en constante evolución en constante mejora

como herramientas prestadoras de un servicio público eficaz y profesional como se ha debatido también en el seno de la ponencia mencionada

coordinación y colaboración por lo tanto queremos en euskadi que funcione

queremos que los políticos sean responsables de los presupuestos que utilizan y manejan queremos en euskadi la transparencia y en las administraciones públicas simplificadas

pero lo que usted plantea señor maneiro no no lo compartimos porque insisto el problema no son las herramientas señor maneiro

los alaveses los guipuzcoanos y los vizcaínos llegamos a un pacto entre nosotros

que dio que configuró políticamente la comunidad autónoma de euskadi

su propuesta no solo se carga ese pacto entre vizcaínos entre alaveses y guipuzcoanos sino que se carga ese pacto entre vizcaínos guipuzcoanos y alaveses con el resto de españa su neocentralismo vasco señor maneiro lo que hace es dar alas a quienes quieren romper

del resto de españa muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

antes que nada quiero llamar la atención sobre el segundo punto de nuestra iniciativa sobre la que nadie se ha posicionado

prefieren no debatir sobre la cuestión pero nuestro segundo punto no habla de la reforma de la lth el primero sí el segundo punto de lo que habla es de la unificación de las haciendas forales lo que defiende es la unificación de la fiscalidad en euskadi lo que habla es de un único sistema tributario en euskadi lo que plantea es

me parece que es absolutamente contradictorio defender

para el conjunto de europa y sin embargo defender dentro de españa cinco fiscalidades diferentes o dentro de euskadi tres distintas a nosotros esto nos parece

conservadurismo rancio que perjudica claramente los intereses de los ciudadanos

negativa a impulsar todas las reformas que sean precisas para modernizarnos internamente y poder disponer de las instituciones realmente necesarias

gala en relación a algunas de las intervenciones realizadas me ha gustado

comparto los principios que usted ha defendido lo comparto estoy básicamente de acuerdo solamente

esos mismos principios de igualdad dentro de euskadi a defender esos mismos principios para el conjunto de españa creo que

muy interesante defender una sola fiscalidad no solamente en euskadi sino en el conjunto de españa defender igualdad de derechos y obligaciones no solamente en euskadi sino en el conjunto de españa sería muy interesante que usted hiciera ese ejercicio porque si lo hiciera llegaría a la misma conclusión o a conclusiones semejantes al menos no comparto en absoluto porque además creo que usted se lo sabe perfectamente

diga que ha sido el grupo socialista o el partido socialista quien ha impulsado este debate este debate lo ha impulsado upyd desde el año dos mil nueve en absoluta soledad

lópez la reforma de la ley de territorios históricos y el señor lópez me dijo literalmente que no se puede empezar la casa por el tejado qué saben ustedes ahora que no sabían

tenemos el mismo entramado tenemos las mismas duplicidades tenemos las mismas ineficiencias ustedes lo que han venido haciendo cada uno de los grupos ha sido ir posponiendo

con la negativa permanente y luego con la creación de ponencias que no trataban de resolver los problemas las ponencias para qué valen en ocasiones valen para una sola cosa

es no todavía no los trabajos de la ponencia

la ley de territorios históricos ya ha sido reformada parcialmente en innumerables ocasiones no no muy parcialmente en asuntos muy menores esto va mucho más allá esto plantea una serie de objetivos muy concretos reducir duplicidades

garantizar la igualdad de los ciudadanos todo esto es lo que venimos planteando y a todo esto todos ustedes se han venido negando permanentemente

esta es la realidad yo no sé cuál es el acuerdo concreto que alcanzaron el grupo socialista o el partido socialista y el partido nacionalista vasco yo no sé cuál es ese acuerdo

que este parlamento exija al gobierno vasco que traiga un proyecto de reforma de la ley de territorios históricos para que a partir de ahí todos juntos podamos debatir y a través de enmiendas hacer posible la mejor

realizó sus trabajos la ponencia de esta legislatura ha venido realizando sus trabajos las posiciones de los partidos políticos son claras no creo que nadie haya cambiado su opinión y por lo tanto lo que no se puede aceptar es que por el hecho de que haya una ponencia viva en fin los demás tengamos que estar quietos parados sin pretender impulsar

nosotros le propusimos a la señora corcuera una transaccional

el grupo socialista no quiere instar al gobierno vasco a nada lo único que quiere es que este parlamento se posicione a favor de la necesidad de reformar la ley de territorios históricos

votaremos a favor efectivamente hay que reformar la ley de territorios históricos en todo caso señor sémper yo hace unos cuantos años tres o cuatro años escribí un artículo que no sé si usted leyó seguramente no cuyo título era muy interesante

el título era es el entramado estúpidos y no me refería a nadie en concreto

el entramado institucional vasco que es absolutamente insólito en cualquier parte del mundo no existe cosa parecida por lo tanto en este caso el problema

tres haciendas tres políticas fiscales doscientos cincuenta y uno municipios o decenas de empresas públicas el problema por lo tanto es el entramado eso que ustedes

espero que podamos sacar adelante esta votación y en todo caso si no sale adelante esperamos la propuesta del grupo socialista para poder debatirla

presidenta vamos a ver señorías euskadi ha tomado un rumbo que no perseguía la ley de territorios históricos en su exposición de motivos y por eso hay que articular

cuáles son las competencias y la financiación en las áreas en las que concurren los territorios históricos y las instituciones comunes y al mismo tiempo tenemos también que articular adecuadamente

los socialistas queremos reservar a los municipios un papel institucional central como base del conjunto del sistema institucional en su condición de institución primaria

al parlamento al gobierno vasco y a los territorios históricos una subordinación que además ha primado desde la creación de esta comunidad autónoma vasca

los debates el de la ley municipal y el de los territorios históricos no pasa absolutamente nada al contrario

por eso para los socialistas la reforma de la ley de territorios históricos debe clarificar funciones y competencias de los territorios históricos

los tributos es decir normalizar de una vez el ejercicio de las competencias armonizadoras que tiene el parlamento y regular la distribución interna de los recursos

de la ley de territorios históricos y por eso los socialistas vascos nos hemos empeñado y estamos trabajando en una propuesta que revise

con los que contamos cómo modernizamos este país y lo ponemos al día cómo hacemos más justo e igualitario más eficiente y más competitivo

porque para los socialistas vascos no es defendible que en virtud de no se sabe qué esencias intocables quienes tenemos los mismos derechos de ciudadanía vasca

recibamos servicios de distinta calidad y de diferente coste en función de que seamos residentes en álava en gipuzkoa o en bizkaia eso no lo entiende nadie

que son ciudadanos vascos no entiendes por qué tienen que ser distintos allá porque residan

los socialistas vascos creemos de verdad que podemos ganar esta legislatura para reformar la ley de territorios históricos y abordar dos cuestiones fundamentales el reparto competencial

nosotros queremos una reforma de la ley de territorios históricos que llegue con unas bases mínimas para el acuerdo entre diferentes con una propuesta abierta no cerrada porque buscamos el consenso la mayoría por eso

una propuesta concreta como les digo abierta que este parlamento va a poder debatir y acordar la reforma institucional interna de euskadi debe tener como objetivo

el gobierno vasco y los territorios históricos porque no se nos olvide hacer país es legitimar sus instituciones y procurar un marco jurídico claro

como responsables políticos miren decía la señora otadui que igual se había perdido en alguna disquisición

han olvidado absolutamente cuál es el acuerdo al que llegamos entre el partido socialista de euskadi el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco lo han olvidado no es una cuestión de que la ponencia y claro no me haga usted la trampa o no se haga usted la trampa porque me lee el acuerdo y claro es que le falta

porque dice la ponencia parlamentaria constituida ponencia que velará y o tomará la iniciativa para que la tramitación de dicho proyecto cuente con la agilidad suficiente de manera que su aprobación definitiva se ajuste al plazo temporal establecido anteriormente treinta y uno de diciembre del dos mil quince

yo también sé que usted es una persona que tiende a leer y a ser leal pero en fin

y luego lamento que bildu se haya ido a ese debate soberanista y constituyente porque de verdad que lo decía también hablaba de la necesidad de reforma su candidato a diputado general por gipuzkoa diciendo que esta ley era obsoleta que no solventaba los problemas que tenían los territorios históricos

pero nuestro interés el interés de los socialistas vascos en esta reforma no se debe a un cálculo político como algún ha venido a decir o como algún portavoz del partido nacionalista vasco ha manifestado de comunicación nuestro interés se debe al escaso interés demostrado por el partido nacionalista vasco y por el gobierno vasco en sacar adelante una reforma igual por miedo a despertar los fantasmas internos de esa formación jeltzale

es un asunto de todos los vascos y de todas las vascas gracias eskerrik asko corcuera andrea eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

nos ha enseñado la patita de cuál es su verdadero fin con esta modificación que yo había dicho en mi primera intervención se agradece de vez en cuando

radicalismo en el planteamiento de eh bildu radicalismo político conjunto de ideas y doctrinas de quienes en ciertos momentos de la vida social

o parcialmente el orden político o científico o moral o aún religioso sí

no sé dónde está el problema el radicalismo democrático

y la república parlamentaria como forma de gobierno no creo que usted tenga ningún problema con ninguna de esas definiciones del radicalismo yo personalmente no y mi grupo le aseguro que tampoco

usted insiste y además me habla de partidismo no sé dónde

en una propuesta de este grupo que dice que las instituciones tienen que ser vertebradoras de país y que creemos que las instituciones de este país necesitan una reforma

a mí me ha gustado porque normalmente yo llevo otro tipo de debates

con el partido nacionalista vasco porque si no es por una cosa es por otra vuelven a traer aquí que no han hecho que sí han hecho que sí han hecho pero no es lo que queríamos

pero no arrojen a los demás las responsabilidades esa es su responsabilidad y es lo que ustedes firmaron con ellos y hoy este debate es verdad que lo ha traído el señor maneiro y es su iniciativa

por lo tanto no sé muy bien cuál es el objeto de su enmienda la sostenibilidad del autogobierno un autogobierno para ustedes usted ha dicho tres territorios y un solo país yo

permítamelo porque tenemos confianza como para poder espero que me lo permita tres territorios una comunidad autónoma y un país que no es el mío eso seguro y la sostenibilidad del autogobierno puede ser que usted

del autogobierno de la comunidad autónoma vasca dentro de una españa federal que es el sistema que ustedes defienden

gracias señora presidenta señor maneiro le buscaré tengo un archivo especial a su nombre en mi casa que se llama archivo maneiro y además

seguro que lo es pero yo creo que no entiende la foralidad señor maneiro de verdad creo que no la entiende creo

es una cuestión de falta de entendimiento pero no pasa nada pero hay otra cosa que deberíamos de entender viendo el debate

es verdaderamente complejo modificar la lth porque aquí las intencionalidades son completamente diferentes pero es que usted no quiere reformar la lth usted quiere cargarse la foralidad

y una nueva mayoría hay una nueva mayoría conformada por el partido socialista el partido nacionalista vasco y upyd que quiere también reformar y restar restar poder a los entes forales en este caso a las diputaciones algo de lo que nosotros estamos radicalmente en contra

en la capacidad política y de gestión de los entes forales es más de los ayuntamientos también es más queremos acercar la gestión política administrativa más al ciudadano ustedes quieren

quieren recentralizar euskadi la nueva mayoría recentralizadora de euskadi

a las instituciones forales y centraliza euskadi en vitoria nosotros creemos insisto

no con el modelo que ha sido un modelo de éxito en estas décadas

a mejorar la calidad de la prestación que las instituciones en este caso las diputaciones forales prestan al ciudadano y la señora corcuera se preguntaba

por qué tienen que ser distintos uno y otro territorio hablando de la fiscalidad entre otras cosas

muy sencillo porque no son iguales porque álava tiene una singularidad diferente

y diferentes a las guipuzcoanas porque las instituciones forales permiten precisamente responder a esa singularidad de una manera más acertada porque acerca el servicio y acerca la administración al ciudadano

por qué nos igual los impuestos de bilbao o los de vitoria a los de san sebastián

son diferentes por qué deberían de tener posibilidad o tienen posibilidad las diputaciones forales de hacer una política diferente

porque la realidad a la que se enfrentan es diferente entienda usted la pluralidad de euskadi como algo positivo no como algo a cercenar

y rechacemos la homogeneización señor maneiro su proyecto el proyecto de upyd de cargarse las diputaciones forales lo que hace es dar alas a los nacionalistas y a ese proyecto de una euskadi unida y una euskadi separada de españa